de los puertos al país vasco vamos a tener por primera vez una ley de puertos una ley de puertos que hemos pactado yo creo que entre casi todos los grupos

nosotros creemos como todos los grupos que era una ley necesaria hace mucho tiempo

al menos tres o cuatro proyectos de ley fallidos en anteriores legislaturas y en esta ley que evidentemente tiene muchos puntos técnicos

cómo se van a gestionar los puertos y cuál va a ser el sistema de gestión la proposición de ley inicial con la que evidentemente nosotros no estábamos de acuerdo planteaba que el departamento dejara de gestionar directamente los puertos se creaba un ente público denominado kaiak

gestionaría la parte deportiva de esos puertos vascos en el trámite de enmiendas

ese organismo que se creaba ex profeso en el proyecto de ley va a ser el gobierno vasco el que siga gestionando los puertos directamente

como sociedad anónima en lo referente a los puertos deportivos o la gestión deportiva de los puertos va a pasar a ser un ente

con lo cual digamos que se garantiza aún más la gestión

de esa antigua sociedad que se va a transformar ahora con esta nueva ley hemos aprobado y hemos aceptado enmiendas de todos los grupos

y nosotros lo que hemos querido dejar claro en esta ley porque uno de los puntos de debate ha sido el tema de la accesibilidad es que no hace falta repetir la accesibilidad a los puertos porque ya hay una ley de accesibilidad genérica para todos pero bueno está recogida

y nos son digamos sujetos de uso cotidiano de la ciudadanía sino que son para uso de los usuarios

que tienen los puertos entre los acuerdos a los que hemos llegado

que la ley que se va a aprobar hoy y que nosotros vamos a aprobar hoy respeta las competencias

se empeñe en incluir bilbao y pasajes en este proyecto de ley es evidente que no cabe tal y como está establecido en el estatuto de autonomía

y por lo tanto lo único que queremos en este trámite y voy a ser muy breve y voy a acabar es

no vamos a ser la última comunidad autónoma en aprobar una ley de puertos vamos a ser la penúltima después de treinta y seis años repito y es evidente que hay que regular la gestión de los puertos vascos dependientes del gobierno vasco que son casi todos

y lo que esperamos es que con esta nueva ley que se va a aprobar esa gestión sea más eficiente
de lo que ha sido hasta ahora nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

eta akordioan oinarrituta yo creo que era una ley necesaria y buena muestra de ello es que durante varias legislatura se ha venido trabajando sobre esta ley a nadie se le escapa que en ciertas cuestiones ha sido una ley

disensos entre los diferentes grupos de esta cámara pero afortunadamente hoy venimos a aprobar una ley que está basada en el acuerdo que está basada en el consenso

enmiendas presentadas por los diferentes grupos representados en esta cámara y que al fin y al cabo no deja de ser buena muestra de los años que hemos venido trabajando

como decía una ley en la que hemos participado todos los grupos parlamentarios representados en esta cámara todos los grupos habíamos presentado enmiendas que creo

a enriquecer y a mejorar el texto original que venía de la anterior legislatura y creo que esta es una cuestión importante porque si bien es cierto

que también pone de manifiesto que de alguna manera los propios socios de gobierno hemos sabido previamente consensuar los términos en los que se iba a aprobar

tuvimos disensos pero gracias al acuerdo al entendimiento al dialogo entre diferentes quisimos a través de las enmiendas que presentamos en su momento

intentar conseguir lo que hoy va a ser una realidad que es aprobar esta ley porque además eran cuestiones que concitaban el acuerdo de la mayoría de los grupos

por tanto yo creo que es bueno ponerlo de manifiesto que es bueno decirlo y además yo creo que gracias a eso hemos conseguido que esta ley sea una ley mucho más sostenible mucho más racional que se ajuste a las verdaderas necesidades que respeta perfectamente las competencias y que creo que además ponen en marcha una serie de instrumentos que va a hacer de la gestión de nuestros puertos una gestión mucho más eficaz finalmente como decía el representante del grupo popular el señor damborenea

y esa cuestión va a ser directamente gestionada por la administración de euskadi y se crea

que racionaliza mucho más la gestión que ajusta se ajusta a las necesidades y que puede hacer de dicha gestión una gestión infinitamente más más eficaz

representación municipal que tendrán voz en estas cuestiones y que no me cabe duda que gracias a la colaboración interinstitucional

existencia de una ley que como decía estaba demandada por el sector era perfectamente necesaria para una mejor gestión de nuestros puertos

mucho más eficientes y estén gestionados de la mejor manera posible eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

egun on guztioi necesitamos una ley de puertos en euskadi

esta la ley de puertos que necesitamos necesitamos una ley de puertos con más control público con cooperación y colaboración entre las diferentes instituciones

y con más transparencia en la gestión necesitamos una ley de puertos pero no es esta la que necesitamos eta hala esan genuen pasaden otsailean

eskuduna den jaurlaritzako sailari atxikita egongo dela eta gaztelerazkoan berriz adscrito al departamento del gobierno vasco competente en materia de puertos beharko litzakeen bezala

la exposición de motivos el preámbulo de la ley de puertos y transporte marítimo del país vasco que hoy traemos a este pleno para su aprobación y en pocos párrafos

y el mar y la costa forman parte ineludible de nuestro país de nuestro pasado de nuestro presente y sin lugar a dudas de nuestro futuro

de su historia de su cultura de su alimentación y de su economía en general y desde hace no mucho tiempo y del turismo lo que no deja de ser una nueva faceta de la economía siendo por tanto los puertos esos ámbitos de concreción de la actividad económica de la costa

y siendo por tanto los puertos una parte esencial de nuestra cultura de nuestra historia y de nuestra economía en el estatuto de autonomía

se atribuye a la comunidad autónoma del país vasco la competencia exclusiva en materia de puertos siempre que no estén clasificados como de interés general eso

de catorce de mayo que realizó el traspaso de bienes y servicios en materia de puertos

hace hoy exactamente treinta y seis años un mes

en todo este tiempo se han venido gestionando los puertos de euskadi menos bilbao y pasaia declarados todavía de interés general y que nosotros no renunciamos a seguir reivindicando con diferentes normas de rango menor o a través de leyes de otro ámbito como la de tasas patrimonio pesca marítima

aprobar en este parlamento una ley que marque una pauta genérica normativa que lo regule y que los apuntale en sus objetivos para el futuro una ley

y requieren de una regulación más compleja que la de ir aprobando normativas menores parciales ha habido varios intentos y parafraseando al señor martínez cuando el pasado viernes habló de la naval de sestao nuestro grupo

y por diferentes razones a veces espurias las más de ellas

o cuando hemos cogido un barco a motor nos han quitado el combustible necesario para navegar

el gobierno volvió a coger el timón y orientó el barco encontrando suficiente apoyo en el camino para y nunca mejor dicho llegar a buen puerto es cierto que el anteproyecto de ley de puertos de la pasada legislatura tuvo una oposición global y sin entrar a las motivaciones de la misma

y a través de enmiendas poder lograr el acuerdo suficiente para aprobarla hoy esta ley no deja de tener un alto contenido técnico que no voy a describir

pero sí voy a describirles de un modo genérico que por un lado regula la normal actividad de un puerto en sus facetas comerciales y de pesca estableciendo

de hacer que ofrezca estabilidad y futuro por otro lado y ante la creciente demanda del mar como ocio como turismo

establece un sistema organizativo adaptada a este tipo de actividad si la actividad habitual de los puertos

como hasta ahora la propuesta de esta ley para la faceta ocio deporte turismo es que sea a través de un organismo público de derecho privado

en ningún artículo de la ley se crea un chiringuito se crea un organismo público de derecho privado con control público no se ha perdido el control público sigue siendo público lo digo

euskal kirol portua que aun preexistiendo recibe un encargo genérico para gestionar esta parcela

todos los aspectos de esa nueva economía portuaria esta actividad la de la actividad deportiva requiere

requiere de personal en horarios nocturnos fines de semana épocas vacacionales y normalmente no se corresponde con lo que entendemos

requiere de un trabajo específico más parecido a la gestión hostelera y turística lo que nos ha hecho entender que para mejor atenderlo desde la administración pública

la forma óptima era la de organismo público de hecho solo para este verano como ejemplo en los quince puertos deportivos de titularidad de la administración pública vasca se van a realizar veinte regatas de traineras nueve pruebas de natación siete de triatlón cuatro de surf y cuatro de piraguas

diferentes festivales y jolgorios insisto solo para este verano si a ello añadimos el creciente uso de los puertos deportivos con amarres fijos o temporales de embarcaciones de recreos y la gestión que ello comporta resulta que en unos años

que exigía una respuesta de la administración y de este parlamento

y eficaz de un nuevo sector económico que sigue creciendo pero que no puede ni debe entorpecer la tradicional actividad de los puertos esta ley va de eso

y que al tiempo se pueda desarrollar la neoeconomía portuaria sin que la primigenia sufra por ello hay grupos que lo han entendido así

y no puedo pasar por alto nuestro agradecimiento al grupo popular que ha sabido entender la intención de esta ley y que ha sabido aportar

ahora bien hay grupos que a pesar del esfuerzo realizado han dejado enmiendas para este trámite final es legítimo de eh bildu las que han quedado par hoy básicamente un porcentaje elevado de ellas

como entidad pública de derecho privado organismo que se creaba con la ley original pero que desaparecía por las vías de las propias enmiendas del grupo nacionalista y del grupo socialista

pero seguiremos entendiendo como ya he explicado que la parte deportiva requiere de un modelo que no sea estrictamente el de la administración sino dependiente de ella y con agilidad

de la ponencia también eh bildu mantiene algún aspecto sobre el asunto de accesibilidad que independientemente de que ya está regulada en una legislación específica quedó solventado en la misión de una enmienda que recuerda la obligatoriedad de la accesibilidad ya en el artículo uno de esta ley

que los consejos municipales portuarios sean órganos institucionales vinculantes que es una cuestión objetivamente ineficaz y jurídicamente imposible

han sido aceptadas y otras transaccionadas han mantenido unas pocas enmiendas para este trámite entre las que alguna también está relacionada con la no aceptación de este ente público

al tiempo que mantiene alguna que nosotros entendemos no son motivo suficiente para oponerse a la ley aunque cada cual le da la importancia que quiere a los diferentes asuntos

en definitiva de una ley que tuvo ciento noventa y siete enmiendas para el pleno de hoy para su último trámite han quedado veinte catorce de eh bildu y seis elkarrekin podemos reconozcamos que por lo menos el trabajo de limar enmiendas ha sido profundo

hemos llegado a puerto tras treinta y seis años de gestionar la transferencia y desde hoy nuestros puertos tendrán una herramienta legislativa que permitirá que se puedan dar mejor los servicios

para dotarles de nuevas herramientas que les permitan crecer y desarrollarse las capacidades portuarias

y esta ley lo permite hay quienes por poco se han quedado fuera del acuerdo y no se lo recordaré yo se acordarán ellos cuando dentro de un tiempo se den cuentan de que tenían que haber estado aquí

cuatro cosas hay que no podemos recuperar nunca más una piedra tras haberla tirado

el tiempo cuando ha pasado y una ocasión después de haberla perdido nosotros por eso votaremos que sí eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta muy brevemente porque yo creo que hay algunas contradicciones señor becerra usted dice que quiere una gestión más pública y su grupo es el único que mantiene que exista el ente de derecho público kaiak en sus enmiendas para gestionar los puertos vascos

desde la legislatura pasada salvo el partido nacionalista vasco yo entiendo que gestión más pública que la que hace directamente la administración y no a través de un ente público me parece que es más pública y es lo que se produce en esta ley

otra cosa y con el mantenimiento de sus enmiendas y nosotros no podemos estar de acuerdo nosotros hemos modificado los concejos de los puertos para dar entrada

a los usuarios que tienen algo que decir en la gestión de los puertos ahora bien la competencia es del gobierno vasco

es hacer dejación de sus competencias y de sus funciones compartiéndola con

no es legalmente posible ni políticamente recomendable por lo menos desde nuestra

vía la privatización a ver hasta hoy existe una sociedad anónima

que un ente público es más creo que un ente público no se puede privatizar pero claro el resultado de esta ley es que desaparece una sociedad anónima

y por lo tanto yo creo que el tema este de la privatización

de gestión privada en la comunidad autónoma y en todo el cantábrico y en todo el mediterráneo

de gestión privada y en cuanto a los puertos de bilbao y pasajes pues yo puedo entender que usted quiera que estén contemplados en esta ley pero como usted misma ha reconocido no tenemos competencia sobre ellos con lo cual tampoco entiendo que se diga que como no tenemos competencia sobre ellos pues estamos en contra de la ley mientras tanto

no van a tener la posibilidad de poder estar mejor gestionados y a través de una ley eskerrik asko damborenea jauna

laburrean señor becerra es cierto que se han incorporado unas cuantas enmiendas presentadas por su grupo relativas a cuestiones medioambientales

entendíamos que no tenía su reflejo en leyes que

como ha ocurrido con otras enmiendas que abordaban cuestiones que entendíamos que tenían su peso y que tenían su importancia como pueden ser el tema de la accesibilidad o el tema

y que por tanto ya no tenían ningún sentido volverlas a incorporar a esta ley de puertos en tanto en cuanto esa ley pueda aplicarse

esas cuestiones por tanto entendemos que han sido racionalmente rechazadas por esa

sino porque ya están reflejadas en otras leyes como decía el señor damborenea a nosotros también nos ha sorprendido que hayan querido mantener las enmiendas que mantenían

nosotros apostábamos por una gestión directa por parte de la administración pública vasca y por tanto no entendíamos muy bien ese

yo creo que la diferencia es sustancial y si observa el texto original con el texto que hoy se va a aprobar yo creo

reconocer no tiene absolutamente nada que ver el texto original con lo que hoy vamos a aprobar precisamente

público de derecho privado que se va a dedicar a gestionar los puertos ocio de carácter de ocio recreativos los puertos deportivos

no entiendo dónde está la pega dónde puede estar el problema yo creo que la transparencia la fiscalización de la gestión que se vaya a hacer

estricta y además hay instrumentos que así lo van a permitir va a tener un control directo por parte de la administración por tanto no le veo mayor pega al igual que

de acuerdo pero en fin yo creo que tienen un apartado específico tienen herramientas y tienen precisamente un órgano a través del cual van a poder expresar lo que son sus opiniones y está claro que estamos hablando de

ellos también a nivel municipal van a tener herramientas que van a poder gestionar y no me cabe ninguna duda que dentro de la interlocución entre instituciones y precisamente a través de estos órganos

y tenida en cuenta por tanto como decía en mi primera intervención creo que esta ley además de necesaria llega después de algunas legislaturas de trabajo creo que nos podemos felicitar que a partir de hoy euskadi tenga una ley de puertos que es muy necesaria que va a mejorar

la gestión de nuestros puertos y al igual que hacía el señor tellería en su primera intervención a mí también me gustaría agradecer la disposición del partido popular
a la hora de aprobar esta ley eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

la enmienda que mantenemos sobre kaiak su contenido ha quedado desfasado por la forma

irregular diría yo en la que se tramitaron las modificaciones de la ley

mejor que yo y se quejó amargamente cuando se presentó esta ley en comisión

tuvimos que hacer enmiendas sobre un texto que ya sabíamos que iba a estar modificado el hecho de que nosotros hayamos mantenido esta enmienda pues tiene más un sentido político tiene más un sentido político que un sentido práctico ya sabemos que vamos a perder

el ente público de derecho privado que va a gestionar los puertos también podría ser público cien por ciento también podría ser administración ha dicho el señor tellería una cosa extraña y es que viene a decir como que los funcionarios se van a las tres a su casa bueno y qué hacen los bomberos qué hace la ertzaintza

qué hace el personal de zuzenean se va a las tres a su casa no señor tellería puede haber personal puede haber funcionariado puede haber trabajadores y trabajadoras públicas que trabajen en otro horario no se sostiene sobre ese argumento

si creemos que la administración desarrollando directamente esas funciones mejoraría el control sobre cuestiones como la adjudicación de contratos por ejemplo o

las otras cinco que hemos presentado y que perfectamente podrían haber terminado en el texto

algunas que presentó el grupo de eh bildu como por ejemplo las de accesibilidad y las de gestión transparente de los amarres que haya otra ley no quiere decir que por poner en esta ley

ningún problema y me voy a referir a una de las nuestras como es la de la seguridad laboral la necesidad de que la administración portuaria realice la coordinación de la actividad preventiva en materia de riesgos laborales los puertos son unos de los sitios unos de los lugares de trabajo uno de los centros de trabajo

accidentabilidad hay precisamente porque es un espacio en el que trabajan multitud de empresas y multitud de agentes y como he dicho en mi primera intervención el puerto de bilbao que no es uno de los que afecta esta ley ya lleva dos muertos este año

hace pocos años también tuvo varios muertos por lo tanto no hubiera estado de más

igual que no hubiera estado de más incorporar una enmienda para clasificar las actividades los servicios portuarios en servicios generales

no adjudicadles a empresas privadas y

no hubiera pasado nada por hacerlo obviamente nuestra postura va a ser contraria precisamente porque podría haber sido una ley mejor

claro que por supuesto evidentemente me congratulo de que hayamos sido capaces de introducir en el contenido de la ley la cuestión del cambio climático pero es que

era un olvido que realmente

podría tener consecuencias preocupantes porque ya estamos viendo en los puertos vascos cuál es el efecto muchas veces de los temporales cada vez más fuertes y evidentemente había que darle instrumentos o herramientas al gobierno para poder actuar en esa materia con mayor agilidad yo soy el primero que se congratula

sin ningún problema evidentemente tampoco esto nos va a llevar a romper relaciones pero
que quede constancia l menos nada más muchas gracias eskerrik asko

alguien que hasta los diez años de su vida el único puerto que conocía era de descargas

claro yo he entendido que las enmiendas que mantienen de kaiak realmente se podían referir a ekp pero es un esfuerzo voluntarista si kaiak

en el texto original de la ley pero a lo largo de la ponencia desaparece

decae formalmente hablando decae punto otra cosa es que desde un aspecto de voluntad política porque usted la mantiene políticamente yo también la contesto políticamente pero formalmente no tiene ningún sentido que una ley que no se refiere a una cosa que se llama kaiak mantenga diez enmiendas que se refieren a kaiak es que es un sinsentido pero bueno y en cualquier caso señor y señora otamendi básicamente las enmiendas que mantienen se refieren a leyes genéricas de salud laboral

o de accesibilidad que quiere que se reflejen aquí para nada

simplemente se recuerda que se tienen que aplicar no tienen que volver a remarcarse por eso las hemos rechazado no tienen ningún contenido poderoso rechazarlas o no porque ya están legisladas esas enmiendas que ustedes tienen ya están registradas en otras legislaciones

por cierto hablando de ekp he hablado de horario pero también de servicios usted se ha referido a horarios raros

un festival una regata de remo no es ni de urgencia

no hay algunos ayuntamientos de gipuzkoa gobernados por eh bildu que tienen una empresa pública para gestionar las basuras les parecerá más razonable tenerlo en forma de empresa pública pues a nosotros nos parece razonable fíjese una empresa pública como ha dicho el señor damborenea fácilmente privatizable un ente público imposible de privatizar bueno pues se ha utilizado ese modelo de agilidad

eso es lo que se ha pretendido yo me quedo definitivamente con una cosa

siendo pocas en el fondo aunque las mantengan por un criterio político significa

a este hemiciclo lee detenidamente la ley y las enmiendas se queda con que ustedes se han quedado a esto de aprobar y simplemente no la van a aprobar porque no la quieren aprobar muchas gracias

presidenta consejera señoras y señores parlamentarios buenos días representantes también de las cooperativas que nos visitan buenos días a todos bien seré breve mi grupo presentó al inicio de esta legislatura la proposición de ley

en ley en relación con la presencia de las cooperativas de enseñanza en los consejos escolares de euskadi después de los contactos con el sector

intención en la búsqueda del fomento y la representatividad en la visibilidad de la economía social

esa proposición de ley era obligada y desde luego ha tardado más de cuenta pero en cualquier caso

el objetivo está cumplido los consejos escolares de euskadi es decir el consejo escolar de euskadi y los tres consejos territoriales el de álava el de bizkaia y el de gipuzkoa

van a ver vista enriquecida su composición con la presencia de las cooperativas de enseñanza de los representantes de las cooperativas de enseñanza

existía una insuficiencia las cooperativas de enseñanza no estaban representadas en esos consejos escolares y esta nueva ley solventará esa ausencia

un diecisiete por ciento si tomamos en cuenta todo el sistema educativo vasco no universitario es decir pública y

muy relevantes podemos hablar también de que pueden ser

más de ochenta y dos cooperativas de enseñanza con un total de setenta y dos mil ochocientos cuarenta y siete alumnos y alumnas más de seis mil puestos de trabajo entre profesores trabajadores y personal no docente muchos socios padres

es decir conociendo entonces el peso de las cooperativas de enseñanza en el sistema educativo vasco y después de esos contactos y de la identificación de esa necesidad

presentar esta iniciativa que fue desde luego también aceptada por el gobierno a través del criterio que manifestó que fue tomada en consideración

con aportaciones que también han tenido trascendencia en el texto definitivo es decir se enriquece además el consejo y los consejos escolares de euskadi ya no solo con la presencia de un o una representante de las cooperativas de enseñanza perteneciente a la federación de

sino que también se enriquece después del trámite de ponencia

educativos una persona en representación de la federación de asociaciones de directores y directoras de centros públicos

consejo escolar de euskadi como en los consejos escolares territoriales y también en el consejo escolar de euskadi

a una de las facultades de educación designadas por el consejo del gobierno de la upv

iniciativa inicial de la presencia de las cooperativas de enseñanza en los consejos escolares de euskadi

han identificado han enriquecido esta proposición de ley van a enriquecer la composición de los consejos escolares y en ese sentido nosotros consideramos que es un paso adelante el cubrir esta insuficiencia esta ausencia en ese sentido

como autores de la iniciativa y asumir

pues votaremos a favor de esta iniciativa y desde luego felicitamos también a las cooperativas de enseñanza esta nueva andadura dentro de los consejos escolares no cabe

sí brevísimamente para efectivamente manifestar la importancia cualitativa

invito a la señora ubera a que haga una última reflexión y vote a favor es decir ninguno de los argumentos de la no asunción de otro tipo de enmiendas que su grupo ha planteado impiden que esté su grupo de acuerdo con el planteamiento

escolares con la presencia de las cooperativas de enseñanza además de la universidad

yo creo que ese es el elemento fundamental la clave fue el objetivo inicial de la iniciativa que presentó el grupo popular está bien claro que hay elementos

seguramente analizados y que lo podrán ser en el futuro si anuncian nueva normativa educativa nuevos debates sobre educación

general pero yo también estoy en desacuerdo con la obsolescencia de leyes aunque sean del ochenta y tantos en ese sentido yo creo que no hay más que ver cuál es la composición

se ha nutrido de más capacidad de eficacia y de efectividad

una buena ley muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias presidenta esta ley que hoy modificamos

no universitaria y se configuró como un órgano superior consultivo

está compuesto por una función principal y esa es la de la participación la de todos los sectores de la comunidad educativa y ahora se ha debatido a la toma en consideración de la modificación de esta ley

y nosotros votamos lógicamente a favor de esta modificación esta ley a la que hemos votado actualiza la actual configuración tanto la del consejo escolar de euskadi

esta modificación se hace a instancias de las cooperativas del movimiento cooperativo porque no estaban representados en esta ley no formaban parte del consejo escolar de euskadi

que además era por cierto el objeto principal del grupo proponente entendíamos en su momento y seguimos entendiendo que es adecuado y además muy conveniente esta inclusión

y es cuando menos extraño que no estuvieran incluidas cuando es un movimiento que agrupa a muchísimos centros de enseñanza con esta modificación se ha corregido esa situación y es por ello que deben tener representación porque forman evidentemente parte

es una mejora sustancial porque ayuda a mejorar los propios consejos escolares y a su vez hace una doble función y es enriquecer y fortalecer el sistema educativo se incluye además una representación de las asociaciones de directores y directoras de centros públicos no universitarios de la comunidad autónoma del país vasco y también

los órganos competentes para la designación de los representantes de las facultades de educación de la upv por parte del consejo de gobierno y en su caso

que será en este caso el consejero o consejera que ocupe tal competencia y que en su momento las designe y por último

la perspectiva de género todas estas modificaciones van dirigidas a la correcta redacción de la ley y su actualización y a favorecer la participación de los agentes educativos porque para eso se creó esta ley dar voz a los agentes de la comunidad educativa y para que su conocimiento

ayudasen a mejorar el sistema educativo vasco la ley regula el derecho a la participación y a la responsabilidad de todos los agentes educativos que conforman el sistema y garantiza así la gestión y el control de los centros tenía un objeto muy determinado que era incluir el movimiento cooperativo

a pesar de que otros partidos pedían introducir otros criterios distintos nos alegramos de que haya habido un acuerdo amplio que al final es de lo que se trataba

dejando una representación más equilibrada y proporcional que da cauce a una representación adecuada de todos los sectores se ha intentado

de aproximación especialmente con el grupo parlamentario también del partido popular

para tanto pero nos quedamos con la parte positiva y es que se ha hecho una modificación oportuna adecuada y necesaria

se ha aprobado la proposición de ley de modificación de la ley trece barra mil novecientos ochenta y ocho de veintiocho de octubre de consejos escolares de euskadi

insuficiente pero con la que estamos de acuerdo y por lo tanto hemos votado a favor consideramos que aunque insuficiente es un paso más sobre todo en lo que respecta a introducir una redacción respetuosa con la perspectiva de género la modificación de la ley trece barra mil novecientos ochenta y ocho de veintiocho de octubre de consejos escolares de euskadi se inicia a propuesta del partido popular

artículos concretos de la ley el artículo once y veintidós

un representante de las cooperativas de enseñanza para nosotras esta modificación propuesta no especificaba a que cooperativas de enseñanza concretas se refería por lo que

propusimos la incorporación de una persona en representación de las asociaciones de directores y directoras de centros públicos no universitarios de la comunidad autónoma del país vasco es decir de la federación de asociaciones de directores y directoras de centros públicos

dicho esto y como ya hemos dicho en otras tantas ocasiones en elkarrekin podemos no concebimos políticas educativas que no cuenten con la participación activa y real de la comunidad educativa en estos momentos disponemos

implicados en la programación general de la enseñanza no universitaria órgano de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley disposiciones generales y reglamentos propuestos por gobierno vasco sin embargo consideramos que este marco de participación es obsoleto y necesita un cambio profundo

pero no suficientes la ley de consejos escolares de euskadi es de mil novecientos ochenta y ocho

sino más bien una remodelación completa de la ley con un objetivo claro asegurar que la participación de los consejos escolares de euskadi sea real y efectiva afortunadamente la propuesta del partido popular de modificación de la ley trece barra mil novecientos ochenta y ocho de veintiocho de octubre de consejos escolares de euskadi nos ha posibilitado reflexionar sobre uno de los aspectos que deberían de ser prioritarios en la agenda vasca la participación real y efectiva y activa de la comunidad educativa más aun cuando nos encontramos en pleno proceso de elaboración de una nueva ley vasca de educación y todo este proceso nos ha llevado a preguntarnos realmente la integración

en un órgano superior de participación asegura una participación real activa y efectiva el consejo escolar de euskadi es un órgano de participación real qué peso tiene la comisión permanente las decisiones que se adoptan y más importante aún si cabe a qué tipo de participación estamos hablando

no debe ser unidireccional no es preguntar lo que yo quiero no es tener la respuesta correcta no es pedir opinión o consejo o solo responder preguntas la participación no es un maquillaje no es una maniobra política no es manipulación y no es un instrumentalización de la ciudadanía

la participación requiere conversación opiniones contrastes no es un fin es un medio pero tampoco es solo un medio es una filosofía la participación no es resultado final es proceso no es un objetivo

y no es para la ciudadanía es con la ciudadanía participar es un derecho y un deber todas las personas tienen que poder participar y ser parte

a participar se aprende y hay que entrenarse participar es complicado implica compromiso y confianza por todas las partes pero sobre todo

actitud y no solo es una cuestión de aumentar la representación en definitiva hemos votado a favor de esta modificación de la actual ley de consejos escolares pero insistimos
que es necesario repensar la ley en su conjunto mila esker eskerrik asko macazaga andrea euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

consejera consejero parlamentarias y parlamentarios nos trae hoy la aprobación definitiva de la ley de formación profesional vasca y la verdad además de anunciar nuestro voto a favor quiero decir que es un orgullo

y por qué es así porque estamos hablando de algo que es la historia de un éxito la educación es un tema muy complejo en el que muchas veces no logramos las metas que deseamos

tenemos debates encendidos pero en el caso de la formación profesional lo que creo que todos estamos de acuerdo es que

quizá nos precipitemos a llamarlo la historia de un éxito porque lógicamente esto se prolonga en el futuro pero es probablemente la rama de educación de la que podemos estar más satisfechos

muy buena formación profesional en euskadi la implantación de la especialidad dual de la formación profesional dual está consiguiendo más

y la satisfacción y sobre todo el prestigio que está cogiendo siempre lo ha tenido en euskadi pero que sobre todo con estos resultados está cogiendo el prestigio que está cogiendo entre nosotros es algo verdaderamente valorable

está basado no solamente en la empleabilidad sino en las salidas económicas es bien sabido hoy que personas que salen de la formación profesional y consiguen un empleo

bastante más alta que otros que salen de estudios superiores con lo cual es un orgullo hoy que estemos tratando de esto voy a ocuparme ahora de aquellas enmiendas nosotros las enmiendas que hemos presentado

modificación con alguna transacción lógica pero que nunca han perjudicado

y déjenme que les hable de ellas al artículo tres hemos hecho una modificación

como cualquier otra formación debe ser inclusiva entonces hemos pedido y se ha aceptado que se acepte que se incluyan como objetivos de la formación profesional las personas con dificultades de inserción socio laboral entre ellas personas con discapacidad

sé que los números varían entre los que maneja la consejería y los que maneja nuestro grupo pero varían en poco en estos momentos

que tienen dificultades de aprendizaje u obstáculos de aprendizaje en euskadi entre ellos unos dos mil que es el ejemplo que les voy a poner son personas con síndrome de down hablando con los miembros

echaban a faltar salidas profesionales por ejemplo nos decían

que nuestros hijos e hijas pueden cubrir perfectamente que tiene demanda pero a la que les cuesta llegar que es todo lo relacionado con el turismo y con el cuidado de los hoteles y de las habitaciones de los hoteles

todo ese mundo y ven que no tienen títulos que les acrediten para ello les pongo este ejemplo de la importancia que tiene que esos dos mil estudiantes que en estos momentos según nuestros números tiene síndrome de down no voy a decir padecen voy a decir

puedan por medio de la fp acreditarse

hicimos también una modificación al artículo doce que para nosotros también es muy importante miren en el resto de la educación siempre estamos con la discusión con el debate concertado público nos acompaña

de todas las legislaturas y de todas las discusiones pero en la formación profesional es donde menos sentido tiene

la formación profesional al contrario de otras etapas educativas no tienen currículum único no lo tiene

desde formarse como administrativo hasta como dedicarse a la peluquería y la estética hasta ser programador

dedicarse a la mecánica del coche es decir las especialidades son tantas que aquí no ha lugar a que hablemos de pública y concertada más bien

de qué centros dan qué títulos

otros títulos porque el espectro es

enorme podemos hablar cuando los currículums son iguales

entre concertados y públicos o cuando digo diferencia fundamental lo que algunos ven como fundamental se desdibuja lo importante es que sea una escuela administrativa o que sea una escuela de estética o que sea una escuela de automoción o cosas así entonces al artículo no me va a dar tiempo a leer todas las enmienda por lo que veo al artículo doce hemos hecho

que es introducir el contrato programa para financiar aquellos centros concertados

regular en otro tipo de educación todos los pasos que hay que dar para conseguir verdaderamente la financiación se retrasan tanto que hacen

sea muy difícil de abordar con un contrato programa esa financiación que es la misma no se trata de poner más la van a recibir desde el comienzo

en la formación dual hemos pedido también que los centros de formación profesional todos

en el consejo vasco de formación profesional porque

uno de los terrenos educativos donde verdaderamente hay menos posibilidad de debates ideológicos todos los debates suelen ser

entonces hemos pedido que tengan voz y voto asimismo hemos pedido la mejora en la capacitación de la lengua inglesa en el profesorado de los centros de fp porque

ayer tuvimos la presentación de los resultados del instituto vasco de evaluación

la señora consejera y hay un dato que nos reafirmó

saben ustedes que las familias con el isec más bajo y recuerdo que el isec es el índice socioeconómico cultural hará

solo el dieciocho por ciento de ellas dedicaban parte de sus escasos recursos a educación extraescolar en inglés y de eso hemos pasado a que en el año dos mil diecisiete

de las familias con el isec más bajo con el índice socioeconómico cultural más bajo lleven a sus hijos a clases

incluso las personas que tienen menos recursos son conscientes de que el inglés es una herramienta para el futuro una herramienta

dedican parte de sus escasísimos recursos en formar

en inglés a sus hijos y por eso nosotros volvemos a dar esa importancia aquí al inglés en nuestras enmiendas luego hemos

a distancia con lo cual hay otras enmiendas para cambiar la

y voy a aprovechar los últimos segundos en el párrafo que hemos añadido a la exposición de motivos

se hace necesario seguir trabajando para garantizar el derecho a la educación

en particular personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión esta fp podemos decir esta ley de fp es una ley de una fp
inclusiva muchas gracias eskerrik asko bengoechea

proposición de ley de formación profesional que presentamos tanto el grupo nacionalista como el grupo socialista tiene como objeto la regulación y la ordenación del sistema vasco de formación profesional para dar respuesta a las necesidades de la sociedad y del sistema productivo vasco también

basada en el conocimiento la formación profesional aún queda lejos de tener

y para los socialistas el desarrollo de esta ley es una apuesta estratégica también

porque debe de estar más conectada con el mundo empresarial y por desgracia queda todavía lejos de converger con los sistemas de educación y formación de europa

configurándola en la ley de formación profesional del país vasco para que este sistema educativo esté abierto a los cambios sociales y sea integrador del sistema educativo y el empleo

en la construcción europea es darle calidad a nuestro sistema educativo y ante la crisis económica y la desempleabilidad es la mejor respuesta que podemos dar unir educación

avanzar hacia la estrategia dos mil veinte que marcó europa un crecimiento sostenible inteligente

entre los y las jóvenes es especialmente alta la sociedad la vasca especialmente sigue envejeciendo

soluciones porque las previsiones para dos mil veinte anuncian un alto índice de demanda de alta cualificación profesional y un descenso en la demanda de empleo

de nuevos mecanismos y de nuevas estrategias porque por un lado venimos de un sistema de formación orientado a un puesto de trabajo que también es necesario y seguirá siéndolo y por otro se necesita un puesto de trabajo centrado en el campo profesional

de una transformación de las empresas y de las demandas y de un cambio en el modelo productivo porque los trabajadores deben adaptarse con rapidez si no quieren perder el tren

nos enfrentamos a un reto de la empleabilidad de las personas y de la competitividad de las empresas y se debe garantizar el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades sobre todo para aquellos y aquellas que no tuvieron oportunidad de formarse y que se ven en las situaciones más críticas con empleos precarios

los mismos que con el tiempo irán desapareciendo en la sociedad

para contribuir en la competitividad debemos de ser capaces de dar respuestas rápidas a las demandas de los sectores productivos y del tejido empresarial y no solo eso

muchos factores y debemos conjugarlos las sociedades europeas el envejecimiento de la sociedad la alta tasa de desempleo juvenil las cenizas que dejó la crisis las necesidades del mundo productivo la alta esperanza de vida y una necesidad continua de formación

la formación profesional al tiempo que es un motor de desarrollo económico y no es nuevo que para los socialistas la formación profesional siempre ha sido muy importante y una de nuestras políticas y de nuestros ejes de actuación y prueba de ello es la aprobación de la ley uno barra dos mil trece de diez de octubre

y este ha sido un punto de referencia es una ley que se ha ido gestando con todos los agentes educativos nos hemos centrado en las características que más nos preocupaban como puede ser la mejora de la formación profesional que prepare al alumnado de forma integral y le permita acceder con éxito al mercado laboral

las nuevas necesidades y a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas que hacen las empresas

que conjuga el acercamiento de la oferta al mundo productivo esta sociedad del conocimiento requiere de una formación profesional que se configure como un verdadero proceso

porque esta ha dejado de ser una etapa previa a la inserción laboral y ahora se conjuga en un acompañamiento necesario para hacer frente a los cambios tecnológicos y al desarrollo de la productividad

innovación y emprendimiento dirigido a la preparación de las personas que les permita desenvolverse en un entorno desarrollado además impulsa la formación profesional dual

para dar respuesta a las necesidades de empleabilidad que puedan existir en nuestro país se constituyen nodos de red especializados que impulsan el trabajo colaborativo

que tienen relación con la formación profesional a través de lo que se llama órgano superior de coordinación y se crea también un órgano de dirección del sistema integrado de formación profesional para garantizar la coherencia del sistema de formación profesional se promueve la internacionalización de la formación profesional y el impulso de las lenguas extranjeras promoviendo una formación plurilingüe porque el inglés

es el idioma con el que enfrentarse a un mundo empresarial y cambiante es el idioma

nos parece muy importante el impulso al inglés porque además el impulso al inglés no es incompatible ni supone ningún obstáculo

lenguas cooficiales se establece un modelo bilingüe que garantiza lo establecido en la educación secundaria y se establece además un modelo de evaluación de todo el sistema como he dicho antes esta es una ley muy consensuada en la que han participado diferentes agentes educativos

porque hay que darle un impulso a esta enseñanza no solo a la educación en la universidad sino también a la formación profesional

desde el principio que hubiera el mayor consenso posible hemos recogido de hecho todas las enmiendas presentadas por el partido popular es verdad que euskal herria bildu nos planteaba un modelo diferente de hecho presentó su propio proyecto de ley de formación profesional y además uno de los problemas que les generaba la ley era bildu que no le daba el tratamiento suficiente al euskera yo he de decir que sin ánimo de atacar ni no defender al euskera porque los socialistas hemos estado siempre en todas las leyes que lo han regulado y lo han dado impulso

apostar por el inglés sin tener que entender que eso suponga ningún ataque al euskera y porque además las demandas de los alumnos de fp

y no se solicita el euskera como lengua principal para la actividad profesional porque se prioriza el empleo y la capacitación profesional por encima del dominio de las lenguas

o maldad de una ley solamente en función del impulso que se le dé a una determinada lengua en este caso el euskera porque entendemos que hay aspectos mucho más relevantes

para que se puedan enfrentar al mundo laboral y a las demandas del tejido productivo por parte del grupo parlamentario de podemos creo que hemos intentado hacer un esfuerzo importante de acercamiento de posturas para llegar a acuerdos para transar algunas para aceptar es evidente que no hemos tenido éxito porque presentan una enmienda a la totalidad y lo lamentamos aun así agradecemos el esfuerzo que han hecho todos los grupos y entendemos que esta es una ley importante y primordial que necesita salir adelante y de la que los socialistas particularmente nos sentimos satisfechos

admite una enmienda del partido popular en ese sentido pero desde nuestro grupo habíamos reservado una serie de enmiendas que completaban la ley en esta materia que estaba muy vacía de contenido que incluía medidas concretas no una general que nos parece incluso positiva pero que se queda incompleta y que incluía todas las acciones que en nuestra opinión y además en contraste con los grupos que trabajan a favor

concretas que iban a quedar establecidas en la ley medidas de acción positiva como por ejemplo la reserva de plazas en toda la oferta formativa las curriculares etcétera etcétera también

estábamos afirmando que nos parecía excesivamente farragosa y quizás un poco

en este momento que buscaban cierto orden clarificar enmarcar intentar que no diera lugar a confusión porque estamos hablando de términos que aparecen por primera vez en leyes

nuestro país hay términos diferentes como formación para el empleo competencias básicas competencias profesionales cualificación profesional etcétera que nos parecía muy necesario además últimamente en muchas

de artículos que pensábamos que pueden ayudar a clarificar conceptos

en la misma que no fueron recogidas enmendamos y además debatimos tanto en la ponencia como en las negociaciones sobre la red vasca de centros especializados volvemos a decir aquí que lo que conocemos de ello no nos tranquiliza

esta posible creación de dos redes una red de primera de centros de formación profesional y una red

profesional y además con una enmienda muy clara que era priorizar el eje de la red de formación profesional pública que no se introduce no hay ni una sola referencia en este sentido esa enmienda que hicimos no se introduce en la ley y por tanto

viendo el conjunto del sistema educativo vasco pues

de izquierda desconfiemos de las verdaderas intenciones que hay con esta situación

ordenación del sistema vasco de formación profesional hay

sí que se ha consensuado cómo se va a gestionar por parte del gobierno eso es una de las patas de la ley pero es verdad que queda fuera la participación de los agentes sociales y en especial también de los sindicatos

en la ordenación de la formación profesional vasca

introducido también con la formación profesional dual que no tenemos nada en contra de esa formación profesional y que es cierto que los resultados

están siendo buenos y ahí no hemos dicho nada

a desarrollar eso a futuro pero sí que es verdad que introdujimos que la inspección laboral tenía que tener un papel

en el control de los contratos de la formación profesional dual y eso ha desaparecido es verdad que por ejemplo una y aprovecho que mañana también tenemos un debate sobre europa y también

el criterio de derechos humanos en esa materia y en esa enmienda por ejemplo llegamos a un

por tanto con las enmiendas presentadas y con las

esta ley porque como ya hemos dicho anteriormente pensamos que no está a la altura de las necesidades que tienen las personas vascas y tampoco el sistema de formación profesional de euskadi ni siquiera las empresas vascas porque renuncia a cualquier atisbo de dirección

en ese sentido quedan totalmente fuera y lo único que hace es adaptarse al mercado laboral creo que

tendríamos que tener que hacer algo sobre la dirección

únicamente no va a ser la que lo vaya a hacer pero luego tuvimos un debate terminológico casi de los pocos que hemos tenido pero

del bien común en la ley constantemente y casi artículo a artículo hay una palabra

a un acuerdo excepto en una muy concreta es el tema de la competitividad nosotros estábamos haciendo una enmienda que iba en el sentido de la viabilidad de nuestro sistema

en cuanto a los derechos laborales de las personas y la viabilidad empresarial entendida en un sentido mucho más amplio que la sacrosanta

y para las trabajadoras que no es lo mismo que para los que hacen los balances de las empresas y yo creo que define ideológicamente una ley a la que nosotros no podemos sumarnos

y como decía al principio intentamos introducir enmiendas que pudieran ordenar en nuestra opinión humilde opinión

ciertamente con lagunas y con ciertas lagunas en cuanto al orden y la dirección que va a tomar la formación profesional en euskadi

bermatu por todas estas razones no podemos respaldar la ley a pesar de que hemos hecho el señor pastor también ha hecho referencia a ello

enmiendas algunas asumidas otras transadas iremos señalando nuestro sentido del voto como hicimos

no podemos respaldar la ley me parece que ha sido una oportunidad perdida de poder haber llegado a un

del conjunto de los grupos y vuelvo a decir que

en el último pleno igual que ayer en la comisión

la formación profesional o sobre cualquier otra materia en euskadi eskerrik asko eskerrik asko

estamos ante la primera ley estatal de fp

y recoge nuestro propio modelo de fp pero esta ley renuncia a ser una ley vasca ya que no establece las disposiciones para ello

del mandatario de turno al cortoplacismo al albur del mercado sin garantías de liderazgo público

es el primer paso para externalizar la fp del ámbito educativo ya que establece discrecionalmente que el gobierno de turno decidirá el departamento que liderara la formación profesional galdera zuzena da

con el objetivo de hacer realidad un modelo que permita mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas en entornos de gran complejidad una ley que dote a euskadi de los instrumentos que le permitan afrontar de forma solvente los retos planteados por nuestro tejido productivo

que requieren de una mayor preparación y especialización para ello euskadi necesita un sistema de formación profesional flexible con capacidad para adaptarse y cumplir sus fines en una sociedad y una economía en continua transformación esta ley pretende regular y así

el marco en el que deberán desenvolverse las políticas de formación profesional de la comunidad autónoma vasca

impulsando para ello una economía basada en un crecimiento inteligente sostenible e integrador y potenciando a la vez

para eaj pnv el desarrollo de la formación profesional es una apuesta estratégica factor clave para la empleabilidad y a un mismo tiempo motor del desarrollo económico

si tuviese que hacerles la presentación de esta ley les diría que la ley aporta una novedad a la que da cobertura el modelo combinado de formación profesional en el que se integran no solamente el ámbito de la formación profesional integrada sino

los aprendizajes en innovación aplicada en pymes y emprendimiento activo en el ámbito de la formación profesional esos son los tres ejes sobre los que se sustenta el modelo

irán dirigidos a impulsar la realización de aportaciones concretas desde la formación profesional a la cadena de valor de las empresas con el objetivo de optimizar y mejorar sus procesos productivos

orientadas al fomento de la cultura emprendedora y organizadas sobre la base

primer ámbito la internacionalización la internacionalización del sistema vasco de formación profesional es otro de los ejes sobre los que trata de incidir esta ley de forma más trascendental ese proceso de internacionalización se asienta sobre tres tipos diferenciados de intervención

los programas de intercambio de profesorado y de estudiantes en las dos direcciones en segundo lugar la oferta de actividades formativas del sistema vasco de formación profesional en otros países de especial importancia en el caso de empresas vascas con centros de trabajo en el exterior y en tercer lugar lo que se podría denominar la exposición de experiencias del sistema vasco de formación profesional a otros países

aportando el conocimiento y experiencia existentes en euskadi segundo ámbito

el desarrollo a la formación profesional dual se constituye como un objetivo estratégico fundamental para el impulso de un modelo de formación profesional

de formación profesional dual que incluye tanto la formación profesional inicial

demandadas por el tejido productivo en general y de los sectores prioritarios de conocimiento en particular hirugarren alorra landu beharrekoa

en segundo lugar con respecto a la cuestión de las lenguas la formación profesional se ve enfrentada al reto de la extensión del conocimiento de lenguas extranjeras en el mundo profesional

con carácter general pero también en algunos ámbitos en algunos supuestos el aprendizaje de otras lenguas especialmente en el ámbito de la formación continua laugarren alorra

programak ere señoras y señores parlamentarios no quisiera terminar esta primera intervención

sin hacer una reflexión hemos escuchado frecuentemente en esta cámara

no hay ningún tipo de autocomplacencia sin una simple constatación de la realidad si les afirmo que en este momento en el ámbito de la formación profesional estamos a la cabeza de europa y esto es algo que podríamos compartir como orgullo de país tanto los bancos que apoyamos al gobierno como los bancos que apoyan a la oposición tenemos

excelentes profesionales con visión con conocimiento con compromiso y con conciencia de país

algunos representantes creo que están hoy en tribuna y aprovecho para saludarlos

puesto que la formación profesional es el único ámbito de la educación en el que muy al contrario de otros ámbitos no hay confrontación sino colaboración y cooperación

y de las estrategias que deberíamos tener para que este pequeño país pueda ser grande en europa besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

vamos a ver hemos escuchado en esta primera intervención algunas cosas que a mí me gustaría puntualizar yo he dicho en mi intervención que

que han intervenido con gran carga ideológica yo creo que no se refiere tanto la formación profesional sino a cómo se contempla la vida

estamos muy muy muy separados porque vamos a ver cuando se dicen cosas como que esta solo encaminado

etcétera etcétera y que hay otro tipo de educación profesional

a la satisfacción del individuo y a hacer que sea un

dar la vida con distintos con esos recursos indeterminados en un fin concreto que se les han dado yo creo que es que estamos viviendo

desde luego hay muchas cosas que nuestro grupo está dispuesto a incorporar de personas que no comparten nuestra ideología porque consideramos

de que estudiemos lo que estudiemos vayamos a la universidad vayamos a la fp e

tengamos fracaso escolar la aspiración de toda persona que convive entre nosotros y la nuestra misma es tener un empleo porque lo siento mucho pero es que nuestra convivencia

trabajamos contribuimos y tenemos una vida privada donde nos enriquecemos y donde desde luego puede ser que queramos acceder

y es legítimo pedir a las administraciones que proporcionen espacios donde cultivar esas otras aspiraciones personales

la educación tiene desde el punto de vista práctico no desde el punto de vista moral ni desde el punto de vista espiritual tiene como uno de sus principales fines tener un empleo digno que consiga una vida digna donde a través de los impuestos ayudemos al resto de personas que estén en peor situación

y nosotros por lo menos ahí estamos luego vamos a otra cosa que se ha dicho aquí también

da mundua nuestro escenario es el mundo es el mundo y entonces tenemos

nuestra forma de hacer nuestro no sé qué mire los vascos históricamente siempre han sido personas bien valoradas y han sido bien valoradas porque tenían algo que desde luego nuestras aportaciones a esta ley persiguen que es

la excelencia el objetivo que debemos configurar como gurea gurea gurea gurea da gu

ese es el objetivo que debemos incorporar por eso deben ser conocidos los vascos ese debe ser

la excelencia la excelencia internacional que donde como decía el quijote porque

está en el quijote vizcaíno en aquel momento era una forma de llamar a todos los vascos

que nuestra distinción sea la excelencia y por último ya rápidamente una ley

es un territorio acotado con compartimentos donde pueden crecer muchas iniciativas pero si nosotros intentamos meter

en una ley en realidad lo estamos convirtiendo en una jaula y si algún día el grupo de eh bildu con el nombre que entonces tengan

verán como agradecen esta ley porque esta ley mediante decretos mediante desarrollos normativos les servirá para dar forma a las ideas que ustedes tienen sobre la formación profesional mientras que si nosotros tuviéramos una ley absolutamente acotada

nosotros también cuando gobernemos porque les aseguro que llegará ese momento tendrán las manos atadas y tendrán que ir a un cambio de ley que es un proceso mucho más complejo esta ley es un espacio de libertad y de desarrollo y nosotros estamos orgullosos de haber cooperado en ello muchas gracias

con brevedad yo creo que sinceramente señora ubera la postura de bildu ha venido muy determinada porque ustedes habían representado un proyecto de ley alternativo

no les iba a resultar satisfactorio pero no ha sido el grupo socialista ni este parlamentario el que ha dicho que el motivo fundamental para no aprobar la ley es que no se le daba el adecuado establecimiento al euskera han sido ustedes

representantes de bildu en medios de comunicación ponían eso como argumento de fuerza para justificar su rechazo a la ley y sinceramente me parece desproporcionado porque en este campo en el que el objetivo principal es el empleo de las personas de los jóvenes el euskera es un objetivo importante pero no es el más importante yo

pues mire le voy a decir una cosa ya quisiera yo que la ley estatal se parezca a la ley vasca de formación profesional

era el sistema vasco de formación profesional y yo creo que este lo mejora y espero que lo mejoremos todavía más en la ley a nivel estatal que será una de las prioridades

cuando estamos discutiendo de un proyecto de ley de formación profesional vasca conceptos como el euskera y la soberanía territorial también aquí me parece una cierta obsesión señora ubera usted lo ha dicho yo no me lo he inventado usted lo ha dicho en la tribuna y no me parece

o la no bondad de un proyecto de ley en cualquier caso yo reconozco que ustedes intentaron

es verdad que tratando de escorar las aproximaciones hacia su tesis como es razonable pero a partir del momento en que los primero compases vieron ustedes que no se les acompañaba pues no hubo más esfuerzos

dispuesto al menos en parte a asumir determinadas propuestas o determinadas transacciones no las suficientes han entendido pero bueno yo creo que en algo se ha mejorado el texto y desde luego nuestra intención era tratar a acercarnos está claro que no ha sido lo suficiente

en cualquier caso vuelvo a decir como he dicho al principio me parece que es una buena ley que el objetivo fundamental es que nuestros jóvenes tengan garantizado un puesto de trabajo

y de calidad y eso se hace nos guste o no en colaboración con las empresas no supeditados a lo que diga las empresas pero evidentemente en colaboración con las empresas de la misma forma que el departamento de educación tendrá que colaborar también con el departamento de industria a la hora de diseñar el futuro

en base a esa ley y eso no significa que educación deje de tener el papel que le corresponde en el desarrollo de la ley pero es evidente

esta es una de ellas y es algo que recoge la ley y por eso a nosotros nos parece
satisfactorio eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos

las razones pues no veo a la señora bengoechea en este momento pero

en sí mismo y evidentemente la ley de formación profesional que se presenta tiene unas

una dirección muy clara yo sí que me gustaría dejar claro que una cosa es adecuarnos realidad existente y mitigar mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas y otra cosa es renunciar directamente a intervenir en la economía desde el sector público y adaptar esas

mejor empleabilidad a que esas vayan condicionadas a una mejora de las condiciones

de calidad y sin perder poder adquisitivo por eso hablábamos también en alguna de las enmiendas de una formación profesional para una vida digna y por eso también introdujimos una

para que no recuerdo literalmente para que la inspección laboral tuviera un papel preponderante en el control de la formación profesional

una cosa genérica para que el gobierno pudiera aceptar esa enmienda que no se ha aceptado una cosa que es la propia esencia de la inspección laboral pero pensábamos que desde la formación profesional ya que introducíamos conceptos

y una adaptación a la realidad que es la fp dual

a la inspección laboral para que cumpla con su cometido y señor

no confunda que no estemos de acuerdo con una ley con que nosotros estemos criticando a los y las profesionales de la formación profesional a los y las alumnas de la formación profesional no confunda porque muchas veces cuando

más que dos partidos del gobierno cuando el grupo nacionalista vasco es un concepto manido y que se debería estudiar hasta casi en la universidad el principio de realidad del partido nacionalista vasco

y en eso no se lo vamos a aceptar nosotros y nosotras no estamos de acuerdo con el conjunto de esta ley hemos hecho un trabajo de las setenta y uno enmiendas y un trabajo de negociación y he recuperado

la serie de medidas que también proponíamos por nuestra parte después de una reunión que estaba también el señor arévalo en dicha reunión

trabajando la ley también les enviamos siete ejes fundamentales por los cuales nosotros

a respaldar la ley o valorar una abstención general a la ley y la respuesta fue

cuando tuvimos la respuesta que no había respuesta por tanto tampoco hay una sorpresa nuestra en nuestra posición por tanto reitero

en la primera intervención y sobre todo el estar en contra

que hagamos una enmienda a la totalidad al sistema de formación profesional de euskadi le digo porque hay profesionales de dicho sistema en esta sala y para que quede meridianamente claro que una cosa es que no estemos de acuerdo con esta ley y cómo va a ordenar el sistema de formación profesional y otra cosa es que estemos haciendo una enmienda a la totalidad al trabajo de profesionales de este sector y sobre todo también o también al trabajo del alumnado históricamente en euskadi y también al esfuerzo y la labor que la clase trabajadora de este país hace día a día para también

cuando renunciamos también desde los poderes públicos a intervenir en ese mercado laboral eskerrik asko eskerrik asko

kexatuz las ikastolas critican a eh bildu por no consultarles su propuesta de ley de fp

ninguna los que me conocen saben que no me gusta hacer las cosas deprisa y la clave para hacer las cosas bien

y por lo que podría deducir una de las cosas que más estimo es mi tiempo

competitividad y viabilidad mire vamos a hacer un debate dual y le pongo un ejercicio práctico pongamos que usted tiene una empresa y busca la viabilidad de la empresa

supongo que entre los factores de viabilidad cuenta usted con la competitividad pongamos que su empresa no es competitiva

y le reto a que venga aquí a un debate monográfico a explicarnos

falta de ambición falta de perspectiva no está a la altura oiga mire
con permiso del señor viceconsejero amaitzen joan urrutia jauna bai una carta de

el responsable de la formación profesional en europa

desde el principio pusimos dos primeros nombres en la lista el primer ministro de los países bajos debido a su activo papel en la educación y el viceministro del país vasco teníamos claro nuestra elección del país vasco

en respuestas concretas que la fp debe aportar para apoyar a las personas y las empresas y prosperar en un mundo tan complejo

mire solo decirle dos cosas una la mayor parte de sus setenta y uno enmiendas han sido cuestiones semánticas y segunda me da la impresión
de que no ha tenido la valentía suficiente para desmarcarse de eh bildu lo cual ya se lo dije en su día en privado eskerrik asko eskerrik asko

el modelo de estado ha fracasado y está roto el punto de partida es reconocer

que quieren decidir su futuro en democracia libertad y con garantías

qué es lo que hacemos aquí y ahora para poder revertir este esquema volátil de incertidumbres no garantista

cualquier medida de regresión esa es la pregunta eta zentzu horretan guk pedro sánchezen gobernua juzgatuko baldin badugu

momentuak direla euskal herria bildu no se va a despistar ni en juegos dilatorios

o discursos sin ninguna consecuencia y esperemos que ningún actor político caiga en ese juego

orain dela denbora dezente gehiago no se puede imponer el derecho a decidir

no se puede imponer el derecho a decidir oxímoron señor pastor

bi mila bosteko kataluniako estatutua artículo uno cataluña es una nación punto se ha acabado se ha acabado cataluña es una nación y al resto de los artículos ya de sobra porque artículo uno dice que cataluña

izango dela por lo tanto las posibilidades de un nuevo escenario vendrán dadas por lo que hagamos

marca como objetivo pedro sánchez poder llegar a dos mil veinte gure aburuz beharbada denbora gutxi izan daiteke

luze bat suele decirse que la noche es más oscura antes de amanecer

una noche muy larga muy larga y cuando parecía que

cuando el autoritarismo más trasnochado nos retorcía las tripas cuando más arreciaba el centralismo rancio uniformador que veíamos venir y cuando parecía además que teníamos rajoy para rato

aprobándole los presupuestos entonces ocurrió lo que ya no esperábamos pero todos y todas

ocurrió que la corrupción se convirtió en náusea ocurrió que un juez y una jueza

pusieron por escrito en una sentencia lo que la ciudadanía ya sabía que el partido popular no ya tal o cual dirigente sino que el propio partido

había mentido ante la justicia y ahí empezó a amanecer sin duda

primero presionar al partido socialista para que presentara la necesaria moción de censura empujarlos significaba

tuvimos que apretar también al partido nacionalistas vasco amagando con una segunda moción

empujarlo significaba no conformarse con que hubiera un nuevo presidente

no frustraría las expectativas y esperanzas de cambio y esto pasa por estar ahí por hacerle ver cada día sus números

su debilidad no para moverle de la silla sino para hacerle mirar a su izquierda y su derecha porque al fin y al cabo con ochenta y cuatro diputados

que en buena medida hoy la agenda sea otra en el congreso de los diputados

que el diálogo se abre paso y que es posible seguir dando pasos en el proceso de paz en euskadi

en la enmienda que no por casualidad yo creo que hemos transaccionado precisamente los tres partidos

hoy todo el protagonismo político está en lo que la ciudadanía vasca lleva meses y meses reivindicando en la calle

en denunciar las violencias machistas hoy también es posible avanzar hacia cuestiones que hemos debatido en reiteradas ocasiones en este parlamento

o dar un trato humanitario a las que están gravemente enfermas

la verdad es que este amanecer en el que todos y todas tenemos que trabajar para que no quede en un destello fugaz de claridad

en política nada puede darse por seguro el más fuerte puede caer

hay momentos como cuando está en cuestión la propia dignidad de las instituciones que preguntarse qué hay de lo mío

se han quedado descolocados ahora toca construir en positivo el reto es ver cómo podemos construir una agenda política en la que la ciudadanía salga beneficiada

ese modo de hacer política toca dejarlo atrás arrinconarlo para siempre y abrir otro en el que la transparencia el bien común y la coherencia sean la norma esto no lo planteo como buenismo no lo planteo como un brindis al sol es que no queda otra cuando la geometría sobre la que se sustenta un gobierno es tan frágil tan diversa y tan plural

o no se dura mucho así que más nos vale a todos y todas que entendamos esto cuanto antes orain positiboki eraikitzeko momentua da hiritarrentzat

las expectativas depositadas por la ciudadanía en este nuevo tiempo político que se abre son muy grandes

ha sido la noche que dejamos atrás el grado de exigencia que tiene el gobierno de pedro sánchez es muy alto y por pura necesidad visto lo que podría pasar si esto no sale bien va a tener que dejarse la piel en convencer no ya con gestos sino con hechos decía antes que en este caso en el congreso de los diputados allí en madrid unidos podemos tiene

en este gobierno un aliado pero que no es un aliado incondicional

esta misma semana se ha comprobado nuestro compromiso allanando el camino con cataluña con las reuniones que nuestro secretario general ha mantenido con distintos líderes

por eso hace escasos días también hemos presentado veinte medidas que el gobierno de pedro sánchez deberá abordar así como hoy presentamos una serie de demandas

eta baita ere aurkeztu ditugun hogei neurriekin blindar la subida de las pensiones subir las no contributivas

derogar la ley mordaza las reformas laborales eliminar copagos revertir los recortes en educación y sanidad o algo también muy de actualidad

y en todas estas demandas predomina una preocupación lo social

de hecho es el partido más antiguo de españa y el partido más antiguo de euskadi

que ha conseguido desarrollar y consolidar los derechos en este país más allá de cualquier otra fuerza política

bien en cualquier caso nosotros entendemos que estamos en un nuevo tiempo en el conjunto de españa

un nuevo tiempo sobre todo de oportunidades y de responsabilidades de todos y cada uno de los partidos y ese es el que estamos empezando a explorar para que los problemas no se pudran

porque para eso y no para ninguna otra cosa estamos aquí y entendemos que la confluencia de intereses que respaldaron la iniciativa socialista de cambiar el gobierno apela directamente a nuestro partido y al grupo que represento y también a quienes quisieron que se cambiaran las orientaciones políticas en españa

los socialistas vascos tomamos la iniciativa desde el primer minuto desde nuestro más profundo compromiso con el autogobierno que hemos contribuido a desarrollar tanto o más que nadie

de que hay que asentar un espacio de convivencia tarea aún pendiente mientras exista alguien en la calle o en la cárcel que se siga sintiendo orgulloso de un pasado de asesinatos y de amenazas y decía que tomamos la iniciativa

a las personas que tienen la responsabilidad en cada área de la agenda pendiente en euskadi para que el nuevo gobierno de españa tuviera actualizadas esas cuestiones de las que hablamos hoy y otras

porque insisto asumimos nuestra responsabilidad de eso veníamos a hablar aunque ustedes han presentado una especie de propuesta camuflaje

desde el gobierno vasco que compartimos el lehendakari ha sido el primer expresidente en ser escuchado en la moncloa en esta etapa el mismo día

sobre las materias que compartimos y hoy mismo ha hecho lo mismo con la consejera de justicia por último ha sido también este lunes haya a quien no le guste esta figura ha tomado como posesión

jesús loza viejo conocido de esta casa con un perfil determinado y reconocido por su capacidad de cosechar confianzas y desatascar conflictos tenemos por tanto bien trazado el camino para aprovechar esas oportunidades que se nos presentan a todos conscientes

que el gobierno de españa tiene sobre la mesa nuestras cuestiones específicas es verdad pero también otras que no son específicas de euskadi pero que nos atañen directamente

corregir los desmanes en derechos laborales los desmanes en la protección del derecho a la salud los desmanes gravísimos desmanes en la garantía de la igualdad plena

los desmanes que han puesto en peligro la sostenibilidad de las pensiones públicas dignas todo eso no son cuestiones específicas de euskadi pero nos afectan tanto como al resto de españa todo esto y aunque haya en esta cámara quienes no quisieran que esos asuntos dependieran de las decisiones del gobierno

también nos afecta y también tenemos que defenderlo conjuntamente todos los partidos que respaldamos

nos equivocaríamos si quisiéramos centrar el foco solo en una parte muy concreta de nuestros asuntos pendientes porque eso también

centremos el foco en lo que más nos une que son los derechos sociales

que sabemos que nos dividen pero ustedes han tomado

con el desarrollo pleno del mejor instrumento que jamás hayamos tenido en nuestra historia para progresar en un proyecto compartido de profunda vocación social ese proyecto

con lanbide con la rgi con la escuela pública con el derecho a la vivienda un proyecto inacabado es verdad en la que todos también tendremos que asumir la cuota de culpa que nos corresponda y nosotros por supuesto

todos quienes hayamos tenido responsabilidades en el gobierno de españa pero también actitudes pasadas del nacionalismo que sembró la semilla de las desconfianzas y llego incluso a contar en ese camino con alguna fuerza que hoy está integrada en elkarrekin podemos

sin revisar su propia cuenta que también la tienen ustedes la que tienen pendiente de explicar a la ciudadanía en todos los años que buscaron el acoso y el derribo de ese estatuto de gernika que ahora formalmente

terminados los reproches lo que cada cual podamos hacer a otros esta moción se relaciona con algo muy concreto con el nuevo tiempo que una mayoría en el congreso que es incluso una mayoría más amplia en esta cámara y que viene a confirmar la vía que quisimos abrir cuando firmamos

de euskadi y digo con total sinceridad que nos habría gustado que se hubiese entendido y atendido por el anterior gobierno de españa lo que hoy vamos a reclamar aquí no ha sido posible pero ya tenemos un recorrido hecho tenemos un informe de actualización de transferencias pendientes que tiene en cuenta la doctrina constitucional desarrollada en estos años

es sobre la que queremos ganar en eficacia y eficiencia a la hora de prestar servicios a la ciudadanía ese es el afán último que nos mueve y junto a ello dos grandes transferencias más complejas por su alcance

de la seguridad social vamos a hablar de ello porque se ha recuperado la vía del dialogo tan necesaria en democracia y tan despreciada en los últimos años y lo vamos a hacer también en un ámbito

otra política penitenciaria que propicie el fin último que buscamos que es que quienes en su día mataron asuman que no debieron hacerlo que es lo que propicia su reinserción y la base sobre la que construir la convivencia futura por tanto es verdad hay un nuevo tiempo en españa hay nuevas oportunidades pero la posición conocida

en la oposición en euskadi y en el gobierno de euskadi en la oposición en españa y en el gobierno de españa es que hay que seguir mejorando la convivencia repito que todo esto es el proyecto que tenemos los socialistas no es ningún pago a nadie antes de que me lo digan

que es lo que se alimenta de forma irresponsable por quienes perdieron en el congreso de los diputados la moción y mi grupo quiere aprovechar para invitar al pp expresamente

y a este camino cuestionar que se cumpla el estatuto es dar la razón a quienes han intentado derribarlo cuestionar otra política penitenciaria con la misma legalidad

y del que nosotros nunca le pedimos cuentas no hay mejor mensaje que pudiesemos trasladar hoy a la ciudadanía que todos los grupos respaldásemos el cumplimiento íntegro de la ley y el diálogo para resolver conflictos es la mejor manera que creemos los socialistas que existe para prestigiar nuestro estatuto y nuestro estado

zergatikan treinta y nueve urte pasa dira eta orduko

nora iritsi nahi duzue kontu honekin me preguntaba el señor pastor a dónde queréis llegar

señor consejero reconocerle al señor urruzuno

de esta iniciativa aunque ahora vaya a ser o haya sido matizada a través de una enmienda de transacción creo que usted ha situado perfectamente

no me cansaré porque además creo que es justo que usted al menos habla con franqueza y con transparencia absoluta de cuál es la voluntad y la intencionalidad que tienen

que la política nacional les parece muy seductora porque pasan cosas pasan muchas cosas

en la misma noria con el mismo raca raca pues parece que hay que mirar continuamente a qué sucede en madrid porque esto

alimenta y da más juego político para ser ustedes tan nacionalistas hablan muchísimo de españa es algo que a nosotros no nos preocupa no nos supone ningún problema

tenemos muchos retos que afrontar muchas respuestas y muchas soluciones que dar a los ciudadanos ante innumerables preguntas y resulta que nos dedicamos a hablar

en lugar de hablar de los problemas y de controlar al gobierno que se sienta aquí

por eso voy a intentar sin ánimo de exhaustividad justificar también por qué no vamos a respaldar

la enmienda de transacción resulta que digo sin ánimo de ser exhaustivo

hablan de regresión democrática como el periodo de los últimos años de gobierno en españa problemas de índole social

y el partido socialista afirma esto un partido que después de dejar el gobierno y españa con cerca de cuatro coma cinco millónes de parados rondando

altos resulta que cuando el gobierno de rajoy es expulsado del gobierno a través de una moción de censura los datos de paro y desempleo en españa son de tres millónes doscientos mil resulta que los problemas de índole social son ahora eran

de personas no ha habido nunca en la historia de españa más mujeres trabajando como ha habido en esta época y resulta que los problemas la problemática social

el gobierno del partido popular resulta que el partido socialista también firma que se tome como referencia en la comisión mixta de combinación del estatuto de gernika el informe trasferencia remitido en el año dos mil diecisiete habrá que explicarle también al ministro de fomento

en materia de puertos en materia de aeropuertos etcétera etcétera etcétera esto es un verdadero despropósito político lo que ustedes han firmado

que sea un tiempo al menos en el que se hable con rigor y en el que no se genere una expectativa y hablaré de esto de la generación de expectativas a continuación no se genere una expectativa que luego va a frustrar a los bien intencionados

algo que nos evoca también a lo que ha sucedido en otros lugares de españa fruto también de la ingeniosa

con nota otro de los puntos que llamaba poderosamente la atención

es este del recurso sistemático a las normas aprobadas en esta cámara ante el tribunal constitucional

esto lo hemos hablado en muchas ocasiones cuando hay una discrepancia entre dos administraciones que lo mismo sucede por cierto en la propia comunidad autónoma en el seno de la propia comunidad autónoma entre competencias conflictos de competencias

discrepancias y no se resuelven también en algunas de ellas a través de los tribunales o es que no ha existido resulta que yo les decía que cuando hay una discrepancia entre dos instituciones hay un árbitro

de sistemas democráticos de nuestro entorno al menos del mundo conocido democrático se llama tribunal constitucional que da la razón a veces a una administración y a veces le da a otra o es que cuando recurre la ley de vivienda de andalucía por ejemplo ante el tribunal constitucional es también una voluntad de vaciar competencias

parte del articulado de la ley de vivienda de euskadi por ejemplo pero que

esto es una vulneración de competencias o una defensa de los derechos fundamentales del ciudadano cuando el tribunal constitucional falla a favor del gobierno vasco por ejemplo

idoneidad de transferir dos vías de dos tramos del ferrocarril en tramo vasco esto también es vulneración de las competencias y es el malvado tribunal constitucional que viene a vaciar de competencias a euskadi bueno esto es como les decía antes un despropósito político

no me voy a repetir vamos a intentar al meollo de la cuestión

que ha situado el punto de partida con esta proposición no de ley y que veremos

para ver cuál es la voluntad real del señor sánchez a la hora de responder a los retos fundamentalmente los retos relacionados con el mal llamado derecho a decidir el derecho de autodeterminación y por lo tanto la independencia de euskal herria

lo ha centrado o ha reconocido que sabemos quién es pedro sánchez claro que lo saben claro que lo saben

me parece que desde su perspectiva y la de estos señores es una ventana de oportunidad magnífica un líder líquido gaseoso débil

entre otros de ustedes y de estos señores para ser capaz de agotar la legislatura y es una oportunidad es

ustedes están esperando que sánchez haga lo mismo que zapatero y creo que tienen muchas posibilidades de que lo haga

muy bueno para ustedes será un problema para los vascos pero quizás sea bueno para ustedes ustedes están esperando una declaración de sánchez

aceptaré y acataré y aprobaré cualquier estatut que salga del parlament ustedes están esperando una declaración de sánchez e insisto creo que lo pueden conseguir

cualquier documento que salga de la ponencia de autogobierno del parlamento vasco en relación con el nuevo estatus con la nueva constitución vasca

este es el escenario que ustedes mejor dicho por ser más riguroso que su gobierno

una expectativa de imposible cumplimiento porque aquí no estamos hablando no les interesa

ni los derechos sociales ni el no no aquí la guerra es otra la batalla que tienen planteada

a la nueva constitución vasca esto es fundamental la piedra angular del movimiento nacionalista e independentista en estos momentos en euskadi lo que sean capaces

y ya sabemos por dónde van y ya sabemos cuáles son los planteamientos ustedes van avanzando con una mayoría que les permite hacerlo así

y ustedes tienen los números para poder hacerlo y han aprobado en solitario

el título preliminar y subsiguientes que aprobarán esto desembocará en la redacción de un proyecto de estatuto que tienen que darse prisa para que el señor sánchez sea presidente del gobierno cuando lo tengan presentado y cuando

esto es el recorrido y el relato y en algún momento la expectativa que está generando el señor sánchez

sino los independentistas en cataluña será una expectativa de imposible cumplimiento hablemos con total claridad y entonces se vendrá a inventar el victimismo el victimismo que tan buen resultado dio en cataluña

en euskadi y esta es la grave irresponsabilidad a la que nos enfrentamos por responsabilidad por culpa del señor sánchez nosotros

le queda alguna duda intentaremos evitarlo muchas gracias

líquido y gaseoso a la vez creo que no se puede ser no sé creo que no se puede baina bueno botatzen zen ideia

talante berria eszenatoki berria tercera vía no sé qué no sé cuántos pero al final acababa haciendo lo que hacía margaret thatcher

excedido repartiendo reproches seis minutos de hecho pero bueno

esta moción por un lado sale con la transacción como se ha dicho evidentemente sale con el apoyo de elkarrekin podemos así como le recuerdo

a unidos podemos que presentó también

y que yo me conservo bastante joven yo creo también hay que tener

a ser irresponsable con algunas cuestiones que se plantean darse cuenta de la debilidad de la que depende con la que cuenta el gobierno de pedro sánchez o de la dependencia que tiene

el no ser consciente de eso eso sí pone en riesgo

que con eso hay que tener mucho cuidado yo me imagino también que no es agradable que a uno le marquen los deberes y menos en una situación complicada

y sobre todo muy claramente y sin lugar a dudas a tener que mirar a izquierda y no a la derecha

desde elkarrekin podemos también le pedimos a unidos podemos en el congreso ni más ni menos lealtad toda exigencia también más aún exigencia para que el gobierno de pedro sánchez no defraude las expectativas que la ciudadanía tiene depositadas en este nuevo tiempo

de momento en estas escasas tres cuatro semanas que lleva pedro sánchez en el gobierno ha habido gestos ha habido muchos gestos

pero también es verdad que tienen que llegar las acciones tienen que llegar los hechos y tienen que llegar las leyes y cuando antes le señalaba yo las veinte medidas que hemos puesto encima de mesa de sánchez es con una finalidad muy clara apoyar al gobierno de sánchez

komentariotxo bat yo creo que evidente que los planes se les torcieron un poco no porque es verdad que en su partido a usted le dieron

la ponencia bueno para sacar el perfil más soberanista yo creo que sobre todo para compensar los pactos presupuestarios en madrid claro ahora aquí no está rajoy y hay que se abre otro

el soberanismo yo creo que les aguarda un viraje en esta materia no digo que de ciento ochenta grados pero yo creo que sí que es verdad que la dirección de autogobierno no es

en estos meses y que todo apunta más a que se va a parecer a otra veremos

porque la verdad es que buena parte de la expectación de cómo se traslada a euskadi este nuevo tiempo político en buena medida tiene que ver con el camino que toma esta cuestión

que lo que se votó el otro día aunque luego tiene un mecanismo automático constitucional fue una moción de censura contra

por eso probablemente fue posible determinadas confluencias porque no hacía mucho tiempo que ustedes habían votado con los señores de podemos por cierto en contra de la investidura de pedro sánchez

los de bildu por lo tanto era más un voto en contra de otro que a favor pero en cualquier caso ese es el gobierno

adelante y yo señor martínez yo no he hecho reproches a podemos solo he constatado que en la época del señor ibarretxe cuando puso en marcha aquel estatuto que acabó en el constitucional izquierda unida formaba parte de aquel gobierno vasco nada más es una constatación histórica no un reproche sin más por lo demás yo coincido con usted en que

consensuar y tirar adelante con la agenda social

yo no sé si es que la proposición de ley se ha hecho para hablar de lo que decía bildu que quería hablar aunque quería hablar de otra cosa o para hablar del psoe

del partido socialista me parece estupendo pero yo quiero recordarle de que el psoe no tiene muy buenos recuerdos el psoe no es de fiar

se puso en marcha una opción de diálogo muy arriesgada políticamente en aquel momento que facilitó entre otras cosas que algunos de ustedes estén hoy aquí por ejemplo y eso

más allá de lo normal y luego hay un tema que ustedes siempre plantean

tenemos que tener nuestra propia capacidad de decisión porque como nos imponen medidas regresivas recentralizadoras y antisociales si lo hacemos desde lo vasco entonces vamos a ser la leche de progresistas pues no la progresividad o no progresividad no depende de que uno lleve chapela o lleve boina

no del marco territorial que nos dotemos esa es la trampa que ustedes quieren vender y somos independientes esto va a ser la arcadia feliz pues no señor

en función de la ideología que inspire el gobierno de turno

yo no me quería meter mucho con el señor sémper porque ha estado moderado ha sido suficientemente inteligente por ejemplo para no hablar de las modificaciones de la política penitenciaria

en el congreso de los diputados volviendo a amenazar con manifestaciones en la calle intentando echarnos los muertos al gobierno como hizo en su día el señor rajoy cuando nos acusó de traicionar

acercó a ciento treinta y cinco presos a este país algunos se excarcelaron y uno de ellos en concreto mató a juan priede concejal socialista de orio pocos meses después

reprochar al gobierno de españa lo que había hecho en la aplicación de lo que entendía que era bien para el país usted dice no no sé por qué ponen ustedes regresión democrática hombre señor sémper porque la ha habido

qué es dejar de invertir en sanidad y en la educación pública más que una regresión democrática qué es cargarse todo el impulso en investigación y ciencia más que una regresión democrática de lo que eran grandes parámetros del estado de bienestar en este país y luego no me haga usted trampa entre sánchez zapatero y lo que ha pasado en cataluña porque el problema de cataluña no se gestó porque en aquel mitin en el palau sant jordi en el que yo por cierto estuve presente

se estropeó cuando ustedes montaron una campaña indecente contra los catalanes en los medios de comunicación y en todas las redes y después llevaron al tribunal constitucional un estatuto que había sido votado por el parlamento catalán y aprobado por los catalanes y ahí empezó

señor sémper para ser justos y mirando a la historia pero eso no se lo digo yo se lo dice cualquier catalán incluso los del pp de cataluña que son poquitos por cierto pero

ser capaz de reconocer lo que ha pasado en esta historia y nosotros aquí lo único que hacemos es exigir el cumplimiento al que ustedes se tendrían que sumar de las transferencias pendientes del estatuto que es lo que se viene a decir se hace también un llamamiento a que el gobierno de españa ponga en el frontispicio de su actuación la agenda social porque aquí también nos afecta aunque no sea agenda vasca y mucho también nos parece importante y se habla de que se puede poner en marcha la modificación de la política penitenciaria algo por cierto

que había que hacer dentro de la legalidad penitenciaria no se está diciendo ahora nada distinto de lo que ya apostó aquel lehendakari

eskerrik asko señora presidenta lehendakari señor pastor un hombre con su experiencia parlamentaria que haya traído ya la réplica preparada

he referido y me habla de debates de ayer en el congreso de los diputados que le aseguro que no he seguido y desconozco pero bueno yo entiendo que

esas técnicas yo lo que le digo es que ustedes están alimentando una expectativa

imposible cumplimiento y que va a generar primero

los independentistas al partido nacionalista vasco y a bildu igual que sucedió en cataluña mire el recurso de inconstitucionalidad es un derecho fundamental es un derecho que tienen los ciudadanos y las

por la propia norma además no nos debe dar miedo porque es garantizar que

esto parece razonable parece razonable que se ha defendido como una herramienta útil y necesaria en política lo que hizo el señor rodríguez zapatero es en buena medida lo que está haciendo ahora sánchez insisto

cumpliría acataría aceptaría respetaría el estatut tal y como saliera del parlament de cataluña eso es una responsabilidad oceánica

a aprobar el estatuto de cataluña ya dice que lo va a respetar sea constitucional o no lo sea

o para quien sea es una responsabilidad política insisto entre otras muchas cosas porque genera una expectativa de imposible cumplimiento

y ni tan siquiera el señor sánchez por muy presidente del gobierno que sea aunque haya sido a través de una moción de censura apoyada por quienes quieren precisamente

catorce este es el gran agravio que se les hizo a quienes lo aprobaron pero artículos además de una contundencia lógica a la hora de ser declarados inconstitucionales es que a ver si les suena porque aquí están haciendo algo parecido a ver si les suena

es decir le dice a los ciudadanos a las administraciones en qué idioma tienen que hablar

no solo constitucional sino me atrevería a decir que ética y moral creaba pretendía el consejo de justicia de cataluña

es lo que han recogido un sistema judicial propio en el cual las instancias acaban

para euskadi esto es lo que es recurrido ante el tribunal constitucional

que han sido recurridos además de la imposición de la obligación a los medios de comunicación en hablar en un idioma determinado cuando los oficiales son dos

todas estas cosas han sido recurridas y habrá que decirlo porque si no parece de verdad que su relato en contra de la actuación del tribunal constitucional es cierto y no ha sido así

en el que y hablando del diálogo mire yo creo que el diálogo no es un fin en sí mismo el diálogo es una herramienta para tomar decisiones para ponerse de acuerdo personas gentes instituciones partidos políticos que piensan de una manera diferente y en su caso acordar algo y ponerlo en marcha

líquido y gaseoso y se puede ser las dos cosas no al mismo tiempo obviamente

líquido o gaseoso en función de su interés particular y de la foto del momento

si baja de un helicóptero o le fotografían las manos es liquido o es gaseoso depende si está

en moncloa o está en el congreso de los diputados es de una manera u otra

va a generar una expectativa y algo que le incomoda o algo que sabe de imposible cumplimiento apela al diálogo como fin en sí mismo

sentémonos en una mesa y ustedes irán y se sentarán y el señor sánchez empezará a dar vueltas

y esto de aceptar y acatar el estatuto que salga del parlamento vasco dialoguemos

vamos a dialogar pero no no dialoguemos y va ganando tiempo y ustedes

lógicamente es un chollo para ustedes el señor sánchez como lo fue zapatero políticamente para quien quiere llevarse saltándose el ordenamiento jurídico e intentando encontrar un presidente líquido o gaseoso es un chollo

por muchos y buenos acuerdos al que se hubiera llegado y por muy buena y

y el gobierno de españa no carente de problemas y discrepancias pero el valor de la palabra dada

la de rajoy no puede ser negada por nadie la claridad a la hora de mantener una interlocución con el gobierno vasco

no la puede negar nadie algo que ahora no van a tener pero lo que ustedes esperan obtener algún beneficio y lo que les he dicho antes en la medida de nuestras posibilidades

pero en un año y medio tampoco es tanto tiempo intentaremos corregirlo para que vuelva la sensatez la serenidad

para que nadie se aproveche del político y responsable de turno en este caso en la moncloa yo les auguro que pronto habrá otra vez un gobierno del partido popular en moncloa lo que será muy bueno para el conjunto de los españoles pero sobre todo